señora presidenta señorías el gobierno de españa apoyado

otro hachazo a las pensiones lo hizo para el año dos mil trece congelando todas las pensiones lo hace para el año dos mil catorce y ahora además con la idea de que esta nueva reforma y este nuevo hachazo

y por tanto se prolongue indefinidamente buscando un sistema de

que vaya permanentemente por debajo de la inflación porque no hay nadie que pueda creer que las cifras barajadas para la revisión de las pensiones pueda estar en consonancia con ninguna fluctuación de la inflación en los años

es evidente que el partido popular tiene su mayoría absoluta para hacerlo pero yo también comparto que no tiene aunque por razones diferentes la legitimidad

es un clamor que la inmensa mayoría de la ciudadanía española así lo rechaza estamos hablando de cerca de nueve millónes de pensionistas y estamos hablando además de un sector que hoy desgraciadamente por la situación económica en muchos casos su pensión tiene que reconvertirla

porque el desempleo está íntimamente relacionado

de esas personas y de esas familias y la ciudadanía española rechaza esto no solamente porque se pierde poder adquisitivo en lo que se refiere a la percepción de la pensión sino porque también se acumula

por ejemplo en el tres coma uno por ciento la cuarta subida en lo que va de año o por ejemplo una inflación que ya va

o una pérdida de uno coma nueve por ciento en el año anterior donde solamente se subieron las pensiones

ese déficit porque además los pensionistas como tantos otros ciudadanos

el cincuenta y cuatro por ciento desde diciembre del año dos mil once hasta hoy y el gobierno del partido popular

la mejor ocurrencia que tiene la mejor política social la mejor política para atender a la ciudadanía y para demostrar la recuperación económica

y en las visitas internacionales plantea que las subidas de las pensiones

por ciento dicen que los ingresos para pagar las pensiones se resienten y efectivamente los ingresos para pagar las pensiones se resienten

los jóvenes tienen que marcharse a otros cuando ya están preparados para poder trabajar y por lo tanto no cotizan aquí se resiente porque se impide el acceso de las mujeres al mercado laboral porque no hay oferta laboral se resiente porque se bajan los sueldos

muchos cotizantes además de una política de igualdad efectiva

se resiente porque con la reforma laboral y con la eliminación de los convenios se fomenta

hay menos cotizantes se resiente porque cae el comercio

económica que ustedes singularmente le llaman recuperación se resiente porque hay demasiados trucos para que algunos no paguen lo que tienen que pagar se resiente porque el dinero de la población se va en buena medida a pagar los intereses de una deuda

nacida y crecida al calor de la especulación y que solamente en el año dos mil catorce

se resiente por la política de austeridad que ha reducido

los cotizantes que hoy tiene la seguridad social por todas estas razones efectivamente hay menos ingresos en la seguridad social y los habrá menos al ritmo de la política del partido popular

de rajoy y sus ministros habrá cada vez menos ingresos en la caja y en las reservas de la seguridad social

yo quiero recordar que en el año dos mil once fuimos deficitarios

que en dos mil doce somos deficitarios

millónes trescientos veinticinco millónes más que en el año anterior casi un veinticinco por ciento más

ocho años siendo deficitarios en el sistema de pensiones y que esto solo puede soportarse un sistema unitario solidario

que es el que en estos momentos opera un sistema solidario

aportan y donde el conjunto de las comunidades reciben por ejemplo en este año pasado han sido madrid baleares y canarias las únicas comunidades autónomas que han tenido superávit en la seguridad social todas las demás

hemos sido deficitarias incluso álava que hace dos años tuvo también superávit en este caso por lo tanto solo se puede hacer

mediante la aportación de todos y mediante un fondo de reserva con ingresos de verdad como es lo que se ha estado haciendo durante muchos años al calor de lo que se llamó el pacto de toledo y de lo que se llama el pacto de toledo

porque también esto ha querido poner en solfa el gobierno del partido popular ninguneando ese de fuerzas políticas y de fuerzas sindicales y sociales para entre todos plantear las reformas a las que deba enfrentarse a las que sean

de todas formas como se insiste en que es posible desde euskadi hacer un proyecto propio de pensiones simplemente me gustaría y lo propongo que quien así lo sostenga

del presupuesto de euskadi y diga exactamente cómo en ese presupuesto puede encajar estos recursos que obviamente le faltan al sistema público de las pensiones en el ámbito del país vasco y por tanto como no da porque hay déficit habrá que complementar

para complementar que la de aportar de los presupuestos y si se va a aportar de los presupuestos

y a la vez quisiera saber esos ingresos de donde saldrían bien esta política del partido popular del gobierno de rajoy

y en euskadi se está trabajando además porque tenga alternativa el acuerdo que se ha suscrito entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista pretende

cambiar la política de austeridad por la política de estimular el crecimiento y el empleo y esa es una alternativa en muchas ocasiones nos hemos manifestado

a derogar esa reforma laboral esa trituradora de empleo y de cotizantes que ha puesto en marcha el partido popular esa es una alternativa también es una alternativa utilizar el fondo de reserva que para eso está no para recortar pensiones sino para acudir en ayuda de las pensiones

y puede haber fondo de reserva si se trabaja bien hay alternativa respetando los acuerdos a los que se llega para reformar las pensiones y revisándolos si es necesario en el pacto de toledo que es el compromiso que todos adquirimos y que el partido popular

con un diseño de política económica fiscal y social similar a que como he dicho antes hemos acordado en estos días en euskadi por lo tanto

una política distinta no es necesario volver a meter el hachazo

no es necesario ensañarse con los más débiles no es necesario ir por el mundo diciendo que nos estamos recuperando y destrozando en buena medida la vida a quienes menos tienen porque además de que ya no les llega para ellos tienen que ejercer la solidaridad

y por eso porque esta política es una política a la que hay que oponerse a la que hay que rechazar hay hoy una posición política mayoritaria en este parlamento que hemos suscrito con el partido nacionalista vasco y en el cual rechazamos este nuevo hachazo y volvemos a reiterar que es en el marco del pacto de toledo en el marco donde hay que hacer las políticas de reforma

o sino mantener las políticas en las que ya anteriormente nos pusimos de acuerdo y por eso hoy es una buena noticia que al margen

se pueda decir aquí habrá una resolución de este parlamento de rechazo frontal a esta medida totalmente antisocial a esta medida absolutamente cobarde porque atenta contra los más débiles y por lo tanto de querer buscar en el diálogo en la negociación y en el acuerdo las alternativas

eskerrik asko berriro presidente andrea berriro arratsalde on guztioi yo la verdad es que estoy un poco sorprendida con la enmienda transacción

manifestaciones de diversos dirigentes nacionalistas el propio lehendakari el propio portavoz del grupo el señor erkoreka pues pensaba que igual se

con bildu reclamando un sistema propio de pensiones pero bueno al final han suscrito un acuerdo con el partido socialista

en esta materia también tienen demasiadas coincidencias

el señor el presidente anterior del partido socialista en el gobierno de españa no tenía mayoría absoluta pues le daba el apoyo el partido

a que se rebajara el sueldo de los funcionarios que luego aquí diligentemente lo llevó a cabo el señor lópez hoy ya presente aquí

y también porque quizás apoyaron también la decisión de congelar las pensiones por lo tanto al final quiero decir que inicialmente estábamos un poco sorprendidos pero que finalmente pues no sorprende tanto porque tienen un recorrido

cuando el partido socialista no tenía mayoría absoluta alderdi popularrak gai honetan berriro berresten du pertsona

conseguir el saneamiento de nuestros mercados financieros que puedan financiarse tengo que recordar aquí que hace un año

prima de riesgo absolutamente desbocada el peligro de un inminente rescate

se han absolutamente despejado y

a la senda de crecimiento y generar empleo estas señorías es la verdadera garantía del sistema

asegurar a todas las generaciones una pensión garantizando un trato equitativo es necesario tener una seguridad social económicamente fuerte capaz de responder

y desafíos a los que se enfrenta la reforma de las pensiones desde luego hay que anticiparla con décadas si aquí se hubiera anticipado quizás una reforma

como estamos porque hay que estar como decía preparados para afrontar los retos y desafíos del futuro el gasto en pensiones ha crecido un ciento ocho por ciento desde el año dos mil y todos sabemos que se incrementa año tras año el número

nueve millónes y cada año se incorpora al sistema entorno a

con la relación que había en otros años en el año dos mil veintidós por cada diez personas en edad de trabajar seis personas estarán

por ello el partido popular ha tenido y está abordando diferentes reformas precisamente para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones

de los diferentes pensionistas es una reforma que tiene como objetivos conservar y consolidar el sistema público

y garantizar la salud financiera de un sistema que tiene que ser autofinanciable y sostenible alderdi popularrak lan egiten du pentsio publikoa

bultzatu dugu gure eredua sendotzeko crear un modelo en definitiva señorías que respete lo más importante que tiene nuestro modelo de pensiones la solidaridad entre generaciones entre los pensionistas de hoy pero también

que son los jóvenes de hoy como decía

dar tranquilidad certidumbre y confianza a los pensionistas de hoy pero también

y también mantener el poder adquisitivo de los pensionistas plazo esos son los adjetivos de las reformas que está emprendiendo el partido popular

de pensiones en cualquier caso se ha aprobado ya la iniciativa correspondiente en el consejo de ministros va a tener una tramitación y yo

constructivas para desde luego hacer entre todos más sostenible el modelo o sostenible en un futuro el modelo de pensiones

un modelo público de prestación definida contributivo y de solidaridad generacional

es importante dar continuidad al pacto

desde luego se garantiza y se pretende garantizar la actualización de todas las pensiones de acuerdo a indicadores objetivos

número de cotizantes ingresos y gastos y se cambia el criterio del ipc porque señorías este criterio ya está en desuso en la mayoría de los países de la unión europea y frente a algunos a los mismos

y que están siempre con su misma cantinela las pensiones

y lo harán en función de la situación económica por lo menos o al menos un cero coma veinticinco por ciento que es el índice de

por lo tanto el sistema público gana en sostenibilidad y queda resguardado de los riesgos demográficos y económicos y desde luego es la garantía

van a subir siempre y se van a blindar de congelaciones futuras

y lo contrario los que vivieron en dos mil once los pensionistas cuando

ya no se van a congelar más las pensiones en españa van a subir y por lo menos un cero coma veinticinco por ciento y señores del partido socialista ustedes tienen el triste récord de haber dejado el sistema de pensiones en déficit pero además por dos veces

dejan la seguridad social como la dejan y luego tiene que venir el partido popular

tienen el triste récord de haber congelado por primera vez por primera vez las pensiones de todos los españoles pero es que además

al fondo de reserva de los excedentes de los años dos mil ocho y dos mil nueve y no separaron como tenían que haberlo hecho las fuentes de financiación

señores del partido socialista si alguien incumplió el pacto de toledo fueron los socialistas

los logros del partido popular o por lo menos los esfuerzos que ha hecho el partido popular en el tema de pensiones

mil novecientos noventa y siete con un gobierno del partido popular para pagar las pensiones puntualmente se han separado las fuentes de financiación

de acuerdo a los presupuestos generales del estado y no se cargue al sistema de financiación también los trabajadores que trabajan a tiempo parcial tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores que trabajan a tiempo completo

se hizo y se ha hecho el esfuerzo de consolidación fiscal más importante en toda la democracia

y no se congelaron como sucedió en el año dos mil once que se congelaron con un gobierno del partido socialista en el año dos mil trece han subido

el resto eso es lo que ha hecho el partido popular y nosotros

creemos que el gobierno del partido popular de mariano rajoy está haciendo lo que tiene que hacer con absoluta valentía

medidas eficaces para superar la crisis y volver a la senda de crecimiento y sobre todo garantizar la sostenibilidad del estado de bienestar y en concreto el sistema de pensiones por eso esta idea la hemos plasmado en una enmienda que es la que hemos presentado

original por lo tanto señor prieto ahí están los hechos lo que ha hecho el partido socialista lo que ha hecho el partido popular y vuelvo a la idea inicial la verdad es que cuando llega el momento de este debate y viendo que hace pocos días el señor

propio de pensiones en el país vasco que ustedes saben que es absolutamente inviable por el déficit existente y gracias señor lehendakari yo le insto a que me presente los datos le insto a que me presente los datos porque

a los pensionistas del país vasco a los ciudadanos vascos que son pensionistas que las pensiones

a lo que se recauda y las cotizaciones de otras partes del resto de españa por lo tanto esa es la realidad señor lehendakari y

sí gracias presidenta hay que reconocer que la señora

bajan a esta tribuna para defender las decisiones del gobierno de españa tienen ciertamente

bueno el resto de parlamentarios también tenemos mucho mérito eso es cierto pero

tiene que ser duro bajar continuamente prácticamente en cada punto a defender

absolutamente disparatadas injustas y absolutamente reaccionarias del gobierno del pp

en fin todas sus mentiras todas sus medias verdades y todas sus tropelías también en este caso con la propuesta presentada para eso que dicen sostener

un absoluto recorte y una medida absolutamente injusta y absolutamente reaccionaria en fin por lo tanto señora garrido enhorabuena porque lógicamente tiene que ser complicado bajar a esta tribuna para defender tamañas medidas

reaccionarias en fin efectivamente tenemos delante una moción de eh bildu que propone que este parlamento inste al gobierno vasco

por el gobierno de españa en relación a las pensiones crear un fondo presupuestario dar los pasos necesarios para disponer de la gestión total de las pensiones y finalmente abrir vías para la participación de las personas mayores

enmienda de totalidad en la queproponemos que este parlamento rechace por injusta la última reforma de las pensiones planteada por el gobierno de españa y

cualquier iniciativa que pretenda reformar el sistema de pensiones yo creo que no se trata tanto de criticar el informe de los expertos que también

la medida política decidida por el gobierno de españa puede haber un informe de expertos un informe técnico pero en todo caso el último responsable tiene que ser el gobierno

el que ha tomado y ha impulsado esta última decisión para la cual por cierto ya tenemos

enmienda de devolución porque efectivamente hemos estudiado a fondo

lo que pretende es impulsar un nuevo recorte contra la mayoría de los ciudadanos contra la mayor parte de los ciudadanos contra la parte más débil

proponemos también que este parlamento muestre su apoyo al mantenimiento y fortalecimiento de un sistema de pensiones digno sostenible solidario público y unitario para el conjunto de españa

necesarias reformas económicas reformas políticas para asegurar una pensión digna

de introducir una dotación presupuestaria es decir la financiación

mantener o con ellas no se pueda mantener un sistema público de pensiones suficientemente digno en fin rechazamos por lo tanto una medida

contra las personas más indefensas una más contra las personas que han cumplido con sus obligaciones y contra las personas que ya llevan tiempo sufriendo

a la decisión política adoptada por el gobierno de españa de plantearnos esta

un cero coma veinticinco por ciento una medida injusta una medida regresiva con la que el gobierno nos condena a un escenario de pérdida del poder adquisitivo de las pensiones de forma

es pedir que retiren la reforma y negocien con el resto de partidos políticos una nueva reforma una nueva forma de hacer las cosas que retiren por lo tanto este disparate en esta enmienda de totalidad que nosotros hemos presentado y que también

que han firmado el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi queremos poner en valor el pacto de toledo porque efectivamente es algo absolutamente

inspira a su funcionamiento control y destino en el llamado pacto de toledo se trata de un acuerdo en el que todas las fuerzas políticas y agentes sociales

cualquier movimiento o cambio en la seguridad social nos parece un buen sistema el objetivo del pacto de toledo era precisamente evitar que las luchas partidistas y los intereses de las siglas se situasen por encima de los intereses de la seguridad

de todas las personas era una manera de consensuar buscar la complicidad de todos los afectados y ser respetuoso con los ámbitos de competencias institucionales

y lo que nosotros queremos poner en valor y hemos querido poner en valor en esa enmienda de totalidad es el sistema público de pensiones una materia de estado elemental fundamental y básica en un estado democrático y de derecho es la base social y fundamental que sostiene el estado

por ello hacemos un llamamiento expreso claro y conciso para que el gobierno español siga los cauces del pacto de toledo vuelva

la seguridad jurídica el respeto a los derechos y al objetivo

de consolidar el sistema de seguridad social por lo tanto rechazo del informe de los expertos pero sobre todo rechazo de la propuesta planteada por el gobierno de españa puesta en valor del pacto y posibilidad de introducir la financiación del sistema de pensiones vía impuestos con el objetivo en todo caso de fortalecer un sistema de pensiones sostenible solidario público y unitario la mejor forma de garantizar una mayor igualdad una mayor viabilidad del sistema y una mayor solidaridad que sea también unitario

inviable y supondría la ruina para miles de pensionistas vascos cuyas pensiones se verían claramente perjudicadas y serían reducidas en todo caso

la gestión del régimen económico no habla del régimen económico asumir el régimen económico tener un sistema propio la capacidad normativa es

asumir la gestión del régimen económico nos traería más problemas que beneficios y desde luego no solucionaría absolutamente nada ya que a día de hoy está perfectamente gestionado de ahí nuestra enmienda de totalidad en relación a la enmienda

en fin se puede decir que ya he comentado cada uno de los puntos que ustedes proponen pediríamos en esta ocasión otra vez la votación por puntos para poder apoyar

por todas las personas de este país también y especialmente por los

no todo el mundo puede decir lo mismo bai eusko jaurlaritzak bai eaj pnvk eta bai gure talde parlamentarioak

qué medidas concretas han tomado o piensan tomar las instituciones gobernadas por eh bildu para paliar esta situación zenbatetan baloratu duzue osagarria

los pasos reales posibles y factibles que podemos dar abandonemos los maximalismos e intentemos dar una respuesta adecuada legal y real a los y las pensionistas pseren legez besteko proposamenari

rechazamos el informe de los expertos de siete de junio informe al que como también

como organizaciones empresariales todos los grupos parlamentarios del congreso y los pensionistas destinatarios de la medida

herritarrak ordezkatzen dituzten erakundeetan egitea eskatzen dugu afrontar la reforma del sistema público de pensiones con los votos de un solo partido

carece de legitimidad material y sobre todo histórica

que siempre han venido precedidas de acuerdos con los interlocutores sociales y acuerdos entre los grupos de la cámara alderdi popularrak esango dit

con diálogo entre los agentes sociales y partidos políticos buscando

como se ha hecho en otras ocasiones porque la comparecencia de la ministra una vez aprobado el proyecto de ley en consejo de ministros qué sentido tiene suena

de toledo esta reforma planteada por el gobierno de rajoy rompe la estructura del modelo actual del sistema público de pensiones los recortes

actuales y futuros para euzko abertzaleak intentar corregir los desequilibrios financieros recortando los derechos de un colectivo vulnerable como el de los pensionistas es un disparate y el colmo de la comparecencia

el hablar de incremento de las pensiones por anunciada subida del cero coma veinticinco por ciento cuando el ipc todos sabemos sube muy por encima de dicha cantidad nos parece terrible

ere beti aurrera por eso a pesar de que a eh bildu le resulte obsoleto exigimos al gobierno del estado que transfiera a euskadi la competencia de la gestión económica de la seguridad social por dos motivos claros y simples uno

y legal aprobado por ley orgánica del estado hace ya muchos años demasiados y que los diferentes gobiernos se han negado a transferir

porque una gestión autónoma de la seguridad social sería mejor ya que cada vez que las instituciones vascas han asumido una transferencia y su gestión la han gestionado con mayor eficacia y eficiencia como se ha demostrado beraz

y si hay que sacar de los presupuestos tendrían que hablar de los números

si alguna vez vino algo positivo del pacto de toledo desde luego hace muchos años que dejó de venir incluso lo poco que quedaba como podía ser el tema del ipc se lo han cargado o sea

hoy aquí y bueno reivindicarlo en este caso desde el pnv

incomprensible a estas alturas eta hirugarren puntua

señora arrondo usted nos propone un sistema propio

yo le digo que quiere ver números y a continuación usted nos contesta no resuélvanlo ustedes en el marco del acuerdo que han hecho hasta hace poco pero claro la propuesta es suya si usted propone un sistema propio

preséntenos los números de cómo se hace exactamente igual que en lo que ha finalizado su intervención

complementaria y además usted dice que son que es una propuesta concreta y posible de hacer

en el presupuesto nosotros estudiamos todo lo que se pueda

en este parlamento no se trabaja ustedes tendrán que hacer su trabajo y los demás haremos

ya sabe que dijo antonio machado aquello de que dos y dos sean necesariamente cuatro no significa que si alguien sinceramente piensa que son otra cosa lo diga porque aquí ya no nos sorprendemos de nada cuando usted baja aquí y lo que dice es que

se van a revalorizar las pensiones usted tiene la cara de cemento y la verdad que hay maquillajes mejores que el cemento para

en un parlamento mire en el dos mil diez y no voy a hacer un debate con usted porque es como debatir con el frontón mire

voy a decir cosas para que queden en el diario de sesiones de esta cámara en el año dos mil diez

subió las pensiones mínimas y congeló las pensiones medias altas

por encima en algunos casos del ipc e inversamente proporcional en función de su cuantía datos del año dos mil diez que son incontestables que están ahí y que solamente la mala fe

o la indocumentación o la suma de todo pueden llevar a plantear

los únicos que han congelado todas las pensiones en la historia de este país han sido ustedes ha sido el partido popular y ahora no solamente

sino que además las tratan de recortar mire en ocho años datos también aquí para que usted diga lo que le dé la gana pero para que queden aquí en ocho años el gobierno del partido socialista

subió las pensiones el cincuenta por ciento en los ocho años del partido popular el veinte por ciento mire hasta en los años malos salvo

se subieron las pensiones en el histórico de treinta años del ochenta por ciento que subieron las pensiones

el cinco por ciento en manos de los milagrosos populares que siempre hacían la gran revolución económica sobraba el dinero cuando ellos llegaban al gobierno

no se les olvida ahora se ceban con ellas ahora las recuerdan para

y meterle los hachazos eso son datos mire fondo de reserva

en este último periodo el fondo de reserva estaba en seis mil millónes cuando nosotros nos fuimos del gobierno

lo que falta ahora es lo que han gastado ustedes en todo este tiempo

mil novecientos noventa y seis y el dos mil cuatro aquel que sus ministros decían que españa iba extraordinariamente bien porque todo el mundo podía acceder a tantos créditos como quisiera

en el fondo de reserva nosotros en los otros ocho años parte de ellos en plena crisis

esos son los datos y son incontestables y mire como usted es la única y exclusiva de la coherencia en el mundo le voy a leer una cosa que está fechada el veintiuno de octubre del dos mil diez que decía los pensionistas tienen derecho a una pensión digna y revalorizada todos los años porque así está en la ley

el veintiuno de octubre del dos mil diez y añadía nuestra alternativa es no robar a los pensionistas eso decía

en esta cámara sabe quién lo decía antón damborenea fin de la cita eskerrik asko

de que las pensiones en un futuro no vayan a bajar ni se vayan a congelar como hizo

por primera vez en la historia de este país el partido socialista obrero español ha sido el único partido que ha congelado las pensiones en este país y no falte a la verdad señor prieto porque en el dos mil trece usted sabe que las pensiones han subido un dos por ciento y la inflación ha sido del uno por ciento y precisamente se desvincula la subida anual al ipc

y en épocas de déficit en épocas como las que ustedes empezaron a conocer en vez de congelar las pensiones como hicieron ustedes repito por primera vez en la historia y tienen ese triste récord no solo de congelar

sino de dejar dos veces la seguridad social en déficit en quiebra hubo que pedir un prestamo cuando llegó el gobierno del partido popular en el año mil novecientos noventa y seis

había dinero eso es lo que hacen los gobiernos del partido socialista dejar las arcas como las dejan pero es que los ciudadanos además lo saben si es que ustedes además

ustedes no separaron las cuentas de financiación si ustedes ya saben cuando me dice usted de

me habla usted de cita yo creo eso además si alguien se caracteriza por ser riguroso y coherente

me consta que muchos escuchan con más atención es el portavoz económico desde el partido el señor damborenea ya que muchas veces ustedes también en determinadas ocasiones además han pedido en alguna que otra ocasión algún u otro consejo

el señor corbacho ya decía que cuando uno se jubila y tiene una merma de sus ingresos el plan complementario pues cubriría el hueco es que eso lo dijo el señor corbacho que fue

el que lo dijo un ministro por cierto del partido socialista

socialista sobradamente pero es lo que han querido los ciudadanos y los ciudadanos después de ver la última gestión del gobierno socialista

y gracias a esa mayoría absoluta que es la que han querido los ciudadanos y gracias

pudiendo hacer reformas absolutamente necesarias

de la situación catastrófica y desastrosa en la que dejaron ustedes

están siendo aplaudidas y gracias a esas reformas se está ganando la confianza

nunca pero se está ganando la confianza de líderes europeos vea las declaraciones que ayer también decía el presidente del banco central europeo vea pues los índices de confianza como están subiendo efectivamente queda mucho camino por hacer pero por lo menos

del túnel con ustedes es que estábamos en la más absoluta oscuridad y al partido nacionalista vasco pues poco me pedía los datos el

los datos la evolución del déficit de las pensiones en el país vasco yo creo que le sonarán

se lo repasamos mucho en los debates de la campaña electoral el déficit y aquí tiene el cuadro y la fuente es la tesorería general de la seguridad social y los datos no creo que hayan cambiado mucho en un año y gracias a la caja única de la seguridad social también se pagan las pensiones de los ciudadanos vascos también se pagan las pensiones de los ciudadanos vascos

perfectamente gestionada que estaba la seguridad social en el estado me imagino que lo habrá dicho con la ironía que le caracteriza porque desde luego los hechos no demuestran eso se habla y se ha hablado que no sería viable el sistema vasco propio

ha quedado demostrado es que no hay ninguna viabilidad en el sistema existente a día de hoy en el estado porque día sí y día también se está echando mano del fondo de reserva por lo tanto la gestión no está siendo nada buena

con los interlocutores sociales y acuerdos entre los grupos políticos y no utilizando la mayoría absoluta hacerlo unilateralmente un partido

esperemos que la transaccional que hemos firmado no se queda exclusivamente en el papel y que a partir de este momento trabajen activamente

para que se materialice la transferencia de la seguridad social cuanto antes saben que en dicho trabajo nos encontrarán siempre

ezta le repito señora arrondo a pesar de que no le guste que para nosotros no cabe los maximalismos las poses en ruedas de prensa criticando al pnv sin hacer propuestas concretas posibles y factibles

viene pidiendo un fondo pero no lo han valorado no tienen ni idea de lo que puede suponer da igual lo lanzan y ya está galdetu dizut

ustedes tienen responsabilidades de gobierno siguiendo ese modelo que nunca concretan en qué consiste pues utilícenlo y den soluciones concretas de cuánto dinero hablamos ni lo saben ni les importa

tampoco importa o no hay respuesta reitero que a pesar de que a ustedes les resulta obsoleta nuestra petición de cumplimiento del estatuto en materia de seguridad social seguiremos reclamándola

y porque estamos convencidos que dicha gestión en manos del gobierno vasco mejorará notablemente baina beti oinak zoruan edukita gustatuko